inbertsioa zein izango zen jakin aurretik como ven no éramos optimistas con lo que el gobierno iba a reservar para el departamento de educación

supone aumentar la inversión en educación en trescientos treinta y nueve millónes y la realidad

el departamento de educación es uno de los departamentos que menos crece este año un uno coma nueve por ciento muy por debajo del tres coma nueve por ciento del conjunto del presupuesto

hacia una educación de excelencia para garantizar el equilibrio social pero al mismo tiempo se nos presenta un presupuesto muy inferior a años anteriores

no alcanza siquiera la cifra de dos mil nueve así

que no nos vendan eso de que el mayor presupuesto con el que ha contado nunca el gobierno vasco o el mayor presupuesto de la historia no es cierto por lo menos no lo es en educación así se lo trasladamos a la consejera de educación en el pasado pleno de control preguntándole cómo era posible hablar del mayor presupuesto de toda la historia cuando en educación

y la respuesta que obtuvimos cito literalmente fue no se pueden comparar los contextos y por tanto no se pueden comparar los presupuestos

el incremento de trescientos treinta y nueve millónes está justificado no es irrealista como les gustaría llamarlo a algunos grupos y es que observando la evolución de gasto en educación el peso del gasto público en educación en euskadi sobre la riqueza ha caído fuertemente en los últimos años se ha pasado del cuatro coma dos por ciento

eta errumania besterik ez zuen bere atzetik un tres coma siete por ciento del pib en euskadi

solo superando a rumania ahora bien nosotros

diga que el gasto público en educación no es comparable pero lo más grave y lo dijimos en el pleno de control lo repetimos en la comisión de presupuestos y lo volvemos a decir hoy aquí no solo nos preocupa cuánto se invierte sino también cómo y en qué y la verdad

bien claro hacia dónde nos lleva este gobierno en política educativa y es que buena parte de lo poco

respecto al año anterior es y cito literalmente para impulsar la mejora de la educación a través de la expansión de los conciertos educativos y nosotros insistimos

es financiando la educación concertada reforzar los conciertos educativos es la manera que tiene este gobierno de mostrar su apoyo a la escuela pública señor pastor

porque al margen del nivel de inversión es primordial asegurar la eficacia y eficiencia del gasto educativo

algo que los indicadores que el gobierno propone son incapaces de medir porque una cosa es invertir mucho en educación y otra bien distinta invertir bien y esto nos lo recordaron los pésimos resultados que obtuvieron en pisa en bi mila hamabost en euskadi

y conviene recordar una vez más que euskadi es uno de los territorios de europa

nos encontramos inmersos en un sistema educativo dual a partes casi iguales

un sistema educativo que camina a dos velocidades que segrega y que parece que para este gobierno

pero que el sector privado concertado en euskadi acoja cerca del cincuenta por ciento del alumnado mientras el estado lo hace el treinta y dos por ciento y la media europea el cinco por ciento

esta situación fomenta una segregación social en función de renta que se traslada al ámbito laboral y de posibilidades de desarrollo personal

y mientras esta situación no cambie la escuela seguirá contribuyendo perpetuar las diferencias sociales y la situación no cambia si se sigue haciendo lo mismo

si se continúa financiando la privatización de la educación si se siguen proponiendo soluciones parche y sobre todo si este gobierno no se marca como objetivo principal

en marcha de un proyecto definitivo y claro para la escuela pública vasca que cuando hablamos de educación parece que les da miedo hablar de escuela pública señora berriozabal que no la mencionan

que este sistema educativo está estancado obsoleto y que necesita cambios profundos no planes que maquillen la realidad hezkuntzako murrizketak ez dira gainditu

los trabajadores no van a recuperar el poder adquisitivo anterior ni con la subida de ese uno coma cinco por ciento de su salario hoy mismo están en huelga el personal de cocinas y limpieza el jueves pasado salieron a la calle el ochenta y seis por ciento del personal de haurreskolak

que llevan desde dos mil tres sin resolver el convenio y que son quienes realmente hacen posible

y el doce de diciembre todos los sectores educativos de la enseñanza pública unidos saldrán a la calle para defender la calidad de la escuela pública vasca calidad educativa que pasa entre tanto por bajar los ratios profesorado alumno y o profesorado grupo

mejorar las condiciones laborales del personal docente y educativo hacer partícipe a la comunidad educativa en las decisiones les afectan o dejar de desviar fondos públicos a la red concertada sin cubrir previamente las necesidades de la red pública y todo ello pasa por invertir más en la red pública porque los recortes se siguen notando en las aulas y en las aulas también se notan los barracones se notan las faltas de recursos

escasas dos semanas se presentó en el parlamento una iniciativa legislativa popular para exigir una escuela inclusiva

vasco una iniciativa que le recomiendo leer porque presenta medidas relevantes para poner cerco a esta realidad medidas como la eliminación de las ayudas públicas en los centros de élite que no alcanza un determinado índice en la atención del alumnado en desigualdad social asegurar la gratuidad de la educación

para hacerla efectiva y hacer frente al fenómeno de las cuotas ilegales o la centralización de la matrícula en oficina únicas por zona entre otras

eta ez sozial giza saltzen badira los presupuestos son realmente sociales cuando cubren las necesidades sociales no cuando se venden como sociales por último

transada con el partido popular de los grupos que sustentan al gobierno una enmienda

y cito literalmente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a presentar unos presupuestos que sigan avanzando en una mayor y más eficiente gestión de los recursos destinados a educación

repleto de movilizaciones y ustedes se limitan a decir que se comprometen a seguir igual precisamente lo que la comunidad educativa está demandando son cambios

desde elkarrekin podemos lo tenemos claro todos los esfuerzos en reforzar la red pública la única opción que puede asegurar la cohesión social pero ustedes claramente todos los esfuerzos los tienen enfocados a seguir igual escuchen a los colectivos y por favor dejen de vendernos presupuestos históricos y sociales mila esker

que hizo elkarrekin podemos y vamos a explicar por qué no hemos podido llegar a un acuerdo con ellos y sí lo hemos hecho con los grupos que apoyan al gobierno miren usted señora macazaga ha vuelto a incluir la palabra en su exposición

todo tiene que ser inclusivo y a mí me llama la atención que una postura que es absolutamente exclusiva porque está usted marginando a la mitad de las familias vascas lo llamen ustedes inclusivo además me parece que dramatizan

mire con un canto en los dientes nos daríamos si la mitad de la población vasca fuera rica no eso no es verdad la sociedad vasca está compuesta fundamentalmente por clase media y la clase media

yo elegí mandarlos a ama guadalupekoa al colegio de la parroquia de hondarribia

y me parecía un lugar adecuado y le aseguro que no tenía ni un duro

entonces no me hagan por favor ese discurso ricos y pobres porque no representa la realidad de hecho en estos momentos en nuestra opinión hay un porcentaje mínimo de la población muy adinerada el resto es clase media en distintos niveles y lo que queda una cantidad importante de la que todos nos debemos hacer responsables en riesgo de exclusión y de esas tenemos que hacernos responsables todos gracias a dios el grueso de la sociedad vasca está compuesta por clase media y las razones que no tiene para elegir la pública o la privada

que fundamentalmente no son de dinero muchas veces es de cercanía yo tengo aquí dos compañeros en mi grupo que han ido a la escuela pública

tenían el centro muy cerca de su casa muy cerca de su casa creo que esa es la razón fundamental

propuesta usted habla de elevar el cinco por ciento fundamentalmente a la escuela pública vasca mire a nosotros

alguna vez con asuntos laborales sabe que los aumentos lineales son fundamentalmente injustos en una empresa donde hay una persona que

si usted hace un aumento lineal del dos por ciento pues que resulta que la que gana mil euros le sube el sueldo veinte euros

el sueldo mil euros es decir los aumentos lineales

injustos yo no voy a cantar maravillas de este presupuesto no lo voy a hacer estoy de acuerdo con cosas que usted ha dicho

que en la comparecencia la consejera nos hablaba del veinticinco por ciento y yo me sentía estúpida porque no entendía qué es lo que estaba diciendo

es decir el peso que tiene el departamento de educación en el conjunto del presupuesto

eso me lo aclaró el viceconsejero porque no lo entendía pero vamos no es ningún consuelo porque es cierto que es un uno coma nueve por ciento y apenas va a llegar para si se aprueba los presupuestos generales del estado para la subidas

maravillas de este presupuesto pero lo que sí voy a hacer y lo tenemos ya preparado es enmiendas concretas no subidas lineales y yo

a ver yo no les animo a nada cada uno ya sabe lo que hace y en total libertad pero

partidas concretas que no nos parecen razonables hacer una enmienda ese va a ser nuestro camino

porque de esa manera cumpliremos con nuestra misión que es controlar al gobierno y uno controla al gobierno no cuando consigue

que tenga un cinco por ciento más de dinero sino controlando si en esta partida por ejemplo la de infraestructuras que está muy mutilada

que verdaderamente se ejecuten yo creo que ya he tocado todos los temas que quería tocar no me voy a extender más

la enmienda que hemos hecho junto con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista

pero ya le digo no porque cantemos maravillas de este presupuesto sino porque nuestra batalla para mejorarlo va a ser vía enmiendas que nos parece

no sé si le he entendido bien qué ha dicho que no va a contar o no va a cantar maravillas

presupuesto yo creo que va usted va más allá

lo que usted hace es apoyarlos y además los facilita que es su derecho

derecho para hacer lo que considere uriarte andrea

gracias presidenta bien hoy debatimos la proposición no de ley

del dos mil dieciocho destinado a la mejora de los recursos de la red pública presentada

en realidad esta proposición no de ley no dista demasiado de la moción que presentó el grupo parlamentario de bildu que debatimos hace dos semanas

bien sea como en este caso destinado a la mejora de los recursos de la red pública y en el otro caso destinado a la investigación de la upv

nos encontramos en el mismo caso o muy parecido se trata de marcar una cuantía fija

de para qué vaya destinada en un caso una cosa en otra otra y como dijimos en el pleno de hace escasamente dos semanas no estamos de acuerdo con esa fijación de una cuantía fija

nos parecerá bien y creo que la comunidad educativa lo recibirá de forma positiva lo que no nos podemos permitir en ningún caso

disminuyese a medida que pasan las legislaturas y se presenten nuevos presupuestos porque nos parece que la educación pública debe de seguir siendo el eje de la sociedad por ello para nosotros para los socialistas lo importante

o marcar el aumento de un porcentaje o de una cuantía en concreto sino que estos presupuestos de los que siempre hablamos sean estables independientemente de quién esté en el gobierno como dije entonces que se fije una cuantía y que cualquier variación del presupuesto

en una disminución del mismo y en este año en concreto yo lo dije en la comisión de presupuestos cuando compareció la consejera el presupuesto crece es verdad que lo hace moderadamente pero crece y a nosotros nos parece una buena noticia y nos parece también una buena noticia algo de lo que no han hablado ninguno de los intervinientes anteriores que se crea

con la interinidad entre los profesionales de la educación que se crea una bolsa de trabajo que permitirá darle estabilidad al profesorado y a nosotros nos parece una magnífica noticia eso junto con el anuncio posterior de poder llegar hasta una convocatoria de cinco mil plazas creo que esa es la cifraque se fija para el departamento de educación creo que no es algo baladí

ni que se pueda dejar de descartar porque por desgracia no en todos los gobiernos autonómicos se está pudiendo hacer el esfuerzo que eso supone

se ha querido hacer por parte del departamento bien es verdad que no suficiente

de mejora evidentemente pero no puedo coincidir en esa especie de discurso apocalíptico

absolutamente mal y de que no tiene enmienda posible porque no es cierto siempre hay un margen para llegar a un compromiso que nos satisfaga a todas las partes

lo que sí es cierto que esta iniciativa se entendería mejor en un contexto

hubiera finalizado y ya no hubiera margen de maniobra pero estamos todavía en el momento oportuno en el que los partidos políticos los que se consideran ahora en la oposición

yo les reitero mi invitación a que tanto podemos como bildu como el partido popular presenten enmiendas a aquellos asuntos o temas que consideren que puedan mejorar o que les resulten de interés y que le den prioridad

para mejorar los recursos de la red pública o para la investigación en la upv como fue el caso de hace unas semanas porque nos parece que iniciativas de este tipo estando a la altura en la que estamos debe de debatirse en primer lugar vía enmiendas antes de la aprobación de los presupuestos

nos parece que en este momento es conveniente y adecuado apoyar la enmienda que hemos presentado conjuntamente con el partido nacionalista vasco y finalmente también con el partido popular

que sigan avanzando en una mayor y más eficiente gestión

porque entendemos que para planificar bien adecuadamente los recursos de la red pública es necesario un buen presupuesto para llevar a cabo muchos retos que tiene la educación pública

para que el sistema educativo sea rico y fuerte probablemente a todos a mí también

el proyecto de presupuestos para los recursos de la red pública en este caso fuese mayor no se lo niego eso es así pero estoy seguro de que también al grupo nacionalista y al departamento de educación pero como he dicho lo importante es fijar un marco estable y para ello apostamos por fijarlo en un pacto educativo en ese pacto educativo del que hemos hablado al menos nosotros muchas veces en las últimas intervenciones sobre el tema de educación en el que sean partícipes

y quiero lanzarles aquí una propuesta un reto como quieran ustedes creo que tenemos que ser capaces todos los grupos políticos de esta cámara y también el gobierno de una vez alcanzado ese gran pacto educativo asumir un compromiso como existe por ejemplo en alemania de que jamás

por las que transite el presupuesto general en educación y en investigación

si fuéramos capaces entre todos nosotros todos ustedes y también el gobierno de fijar ese compromiso político a futuro creo que hubiéramos avanzado mucho en la mejora de la red educativa vasca y especialmente de la educación pública

formalmente y hay que implementar es verdad políticas que pongan a la educación pública vasca como ejemplo y objetivo a alcanzar utilizando con eficacia y eficiencia

que no son pocos porque no debemos olvidar que esta comunidad autónoma es la que más gasta por alumno y en cambio no obtuvimos precisamente los mejores resultados

que es verdad que es una valoración más pero es un termómetro para medir y saber

amplio margen de mejora y yo creo que todos debemos trabajar para que esos resultados mejoren porque como decía antes invertir en educación es invertir en el futuro de esta sociedad

legebiltzarkideok esta iniciativa que estamos debatiendo viene tarde y en estos momentos carece de ningún sentido al igual que las enmiendas que todos los grupos presentamos

el gobierno vasco está actuando con rigor y sigue atendiendo las prioridades fijadas

la educación en toda su extensión y es que tal y como ha afirmado el lehendakari urkullu en diversas ocasiones por ejemplo en el último pleno de política general la educación es un reto de país para el gobierno vasco

baina guztiok dakigu ariketa hori egitea alperrekoa dela ni el entorno económico en el que se contextualiza el presupuesto de dos mil dieciocho ni el contexto presupuestario

por mucho que se empeñen no son situaciones ni contextos comparables euskadin hezkuntza arloan asko inbertitzen da izugarri

así está recogido en el último informe del consejo escolar de euskadi dice así uno de los datos que más llama la atención

ocupa un puesto destacado en comparación con otros países europeos

la incidencia de la dispersión de la población no es determinante en euskadi ya que no es elevada porque el ratio alumno profesor es bajo lo que aumenta el gasto

entre ellos cabe destacar las altas tasas de escolarización las mejores tasas estatales de éxito y fracaso escolar baja ratios de alumnado repetidor altas tasas de personas tituladas y graduadas buenos indicadores de equidad buena atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales formación

etcétera baina asko inbertitzea bezain garrantzitsua da ondo inbertitzea edo modu egokian inbertitzea entendemos que para avanzar en la calidad del sistema considero que todos y todas estamos de acuerdo en nuestro caso no se trata tanto de mayor inversión sino de profundizar en una utilización más eficiente de nuestro personal y recursos como lo han señalado repetidamente expertos educativos internacionales

afirma que en todo caso un mayor gasto educativo no se asocia necesariamente a unos mejores resultados ni a la calidad de la educación además

jarrita eta justizia sozialetik eta ekitatetik aukera berdintasuna bermatuz respecto a la cuantía concreta que elkarrekin podemos pretende incrementar como estamos en pleno proceso de tramitación del presupuesto pueden ustedes presentar enmiendas por el valor del cero coma cinco por ciento del pib vasco del dos mil dieciséis

eso sí no olviden indicar de donde proponen eliminar gasto o inversión por ese mismo importe porque ya saben que para poner dinero hay que quitarlo de algún otro sitio eta gauza bera

genituzke otra cuestión que no quisiera pasar por alto

ocasión de vivir un capítulo más de este empeño y esta obsesión que tienen ustedes con tratar de enfrentar a las redes educativas y esta actitud no beneficia

sinceramente les digo que creo que están perjudicando al sistema en su conjunto

de decirlo nuestro grupo cree en el sistema en su integridad en la complementariedad de las redes y no van a encontrarnos en ese intento

entendemos que se está tramitando un proyecto de presupuestos equilibrado y que a nuestro entender responde adecuadamente a las principales prioridades de la educación

el proyecto de presupuestos garantiza financian suficiente al departamento de manera que siga avanzando en la equidad y la calidad del conjunto del sistema educativo vasco hacia la excelencia priorizando

impulsar la igualdad en el acceso a la educación el impulso a la modernización tecnológica y pedagógica la extensión de los proyectos plurilingües medidas que favorezcan un mayor equilibrio la cohesión social la interculturalidad y la convivencia en los centros la mejora de infraestructuras educativas esas que tratamos día sí y día también en comisión

y por todo ello porque sabemos que ustedes están de acuerdo con estos objetivos prioritarios que tiene marcados este gobierno les pedimos el voto a favor de la enmienda

mila esker bueno señora berriozabal la memoria de los presupuestos ya nos la hemos leído no hacía falta de nuevo aquí

yo no he hablado de ricos y pobres sí que tenemos esa ilusión de la libre elección de centro

ese voluntarismo es ficticio son cuotas obligatorias que las familias

pero seamos sensatos son cuotas que si está concertado el centro son ilegales

con relación a la concertación nosotros no tenemos ningún problema con la escuela concertada señora berriozabal pero quisiéramos saber si en algún momento se ha hecho un estudio de necesidades de qué

y no concertar el universo de centros concertar hasta guarderías privadas o bachiller educación que no es obligatoria y

sí que entendemos una subsidiaria de la otra y eso lo tenemos claro señor pastor no se trata de cuantías fijas

ir recuperando cantidades anteriores a la crisis y presupuestos estables le parece una buena noticia que crezcan medianamente

porque así lo ha reflejado el gobierno el gobierno dijo que esa subida del presupuesto iba dirigida a la expansión de conciertos educativos son palabras del gobierno no las he dicho yo sus discursos me conmueven y me convencen pero luego no veo coherencia en su voto lo siento y señora berriozabal estamos de acuerdo

la educación en toda su extensión habla de realismo no me esperaba otras palabras sinceramente

la consejera decía que no podía compararse ustedes comparan comparan con lo que quieren he expresado unas cifras y es que en europa el pib es el cuatro coma nueve en dinamarca es un siete coma uno y en euskadi es un tres coma siete

o sea cada uno nos comparamos con lo que nos conviene pero yo le agradecería

es el que hemos dejado atrás y si queremos avanzar hay que quitar el espejo mirar alrededor y continuar mila esker eskerrik asko macazaga

por una razón primero porque yo no creo que este sea el mejor presupuesto posible y podemos empezar a dar cifras y datos etcétera etcétera pero por ejemplo en infraestructuras

que el plan de infraestructuras señalaba para este año el gasto de cincuenta y cuatro millónes y en el presupuesto solo aparecen cincuenta y uno por eso les digo que yo no voy a cantar cantar maravillas de este presupuesto

pero lo que sí voy a hacer y además hay otra cosa que me lo pone difícil porque le oigo a la señora ubera e incluso le oigo a la señora macazaga y desde posturas ideológicas muy muy dispares en la que es difícil que estemos de acuerdo en medidas concretas en peticiones concretas podríamos coincidir pero sobre todo he escuchado el discurso de la señora ubera y digo pues desde luego hay cosas desde la disparidad ideológica

coincidir pero qué pasa es que ustedes plantean a nuestro entender un escenario

se segrega porque la concertada es poco menos que una anormalidad que es un privilegio que es no sé qué y ese es un escenario de buenos y malos

porque los padres tienen el derecho a decidir ya que hablamos tanto de eso cómo quieren la educación de sus hijos y luego me hablan de cuotas de cuotas obligatorias

en estos momentos la financiación de los centros va el setenta por ciento para la escuela pública y el treinta por ciento gutxi gora bera porque puede ser treinta y uno etcétera etcétera el treinta por ciento para la concertada es decir ahí no hay igualdad

pero el escenario es ese que el setenta por ciento del dinero va a la pública y el treinta por ciento del dinero va a la concertada y no solamente eso me dicen me podrían decir ustedes bueno pues cosa de ellos no porque una concertada sigue las normativas

todo lo que marca la consejería de educación igual que una pública no son centros privados un centro privado con obedecer la ley en general

está sujeto igual que la pública a las directrices a las normativas a los ratios a todo lo que pide la consejería de educación igual que una pública entonces claro si tiene hay tal desequilibrio en la financiación pues se compensa con alguna cosa por ejemplo el salario de los profesores y a ustedes les oigo defender mucho el salario

y el salario de los profesores en la concertada que es muy muy muy inferior a igual trabajo igual salario hemos oído eso pero claro si el setenta por ciento se dedica a la pública y solo el treinta por ciento

resulta que la concertada está en situación de verdadera dificultad cuando los padres tienen derecho a decidir la educación que quieren para sus hijos y luego ya para terminar señor ubera usted me afea que yo facilito los presupuestos

nosotros solo tenemos un pacto aquí que es el pacto con los ciudadanos y si para los ciudadanos es bueno tener un presupuesto y nosotros creemos que sí nos esforzaremos en que lo tenga es bueno para los ciudadanos

ver aumentada su retribución es bueno para todos es bueno para las infraestructuras

que haya un presupuesto es bueno y por nuestro pacto con los ciudadanos que no es un pacto ni con el partido nacionalista vasco ni con el partido socialista a quien por otra parte como nosotros creemos que en general todo el mundo es bueno o sea no los vemos como monstruos tampoco tenemos ningún problema

yo las firmaría pues nosotros

por qué pues precisamente por eso porque nuestro pacto es con los ciudadanos no es un pacto ni con el pnv ni es un pacto con el psoe es un pacto con los ciudadanos pero sí

no solamente no es una vergüenza facilitar los presupuestos es un orgullo y es un honor muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea

señor pastor parece que hemos leído diferentes presupuesto no sé cuál de ellos habrá analizado la señora celaá me gustaría conocer en estos momentos la opinión que tiene la señora

aukerarik pastor jaunak eskua luzatu dit akordiorako con la palabra de quién me tengo que quedar

alegremente y ya les hemos dicho que no son comparables

el ejercicio que ustedes pretenden hacer podría decirles que en dos mil dieciocho se invierte un porcentaje mayor que en dos mil nueve y es que descontando la deuda el proyecto de presupuestos del dos mil dieciocho representa dos mil setecientos dieciséis coma ocho millónes de euros el veintiséis coma setenta por ciento

y este ejercicio no lo hacen ustedes por algo será por tanto no nos empeñemos en comparar situaciones y contextos que no son comparables

objetivas y contrastables berriro diot asko inbertitzea bezain garrantzitsua da modu egokian inbertitzea y vuelvo a decir que entendemos que en estos momentos con el grado de inversión que tenemos en euskadi para avanzar

más eficiente y hay muchos factores que repercuten en la calidad de los sistemas los sistemas en general son muchos y variados

que ha mencionado la señora macazaga antes antes hablaba de otoño caliente por cierto la temperatura

antes de sentarse a negociar nada datos objetivos que tienen que ver con el personal que tanto se ha mencionado aquí hay un incremento del uno coma ocho en la partida destinada a personal

garantías suficientes para los contenidos que resulten de la negociación de las condiciones laborales que se están llevando a cabo

en sus respectivas mesas cincuenta plazas más de personal laboral para alumnado con necesidades educativas especiales sustituciones desde el primer día también en primaria además de en infantil tres millónes ochocientos mil euros para ello ratios los ratios no solo

acordados con la representación sindical otros datos objetivos acciones de innovación pedagógica

infraestructuras educativas cuarenta y uno coma dos millónes transporte escolar veinticinco coma uno millónes de euros trescientos mil euros más para ayudas al transporte del alumnado con necesidades educativas especiales comedores escolares veintiséis coma seis millónes de euros noventa mil comensales becas no universitarias cincuenta y siete millónes y así podríamos seguir becas universitarias veintiséis millónes sistema universitario vasco cuarenta y uno coma tres millónes investigación cuarenta y siete millónes ess bilbao un millón quinientos treinta y cinco mil euros eta bai ubera andrea berandu dela

muchas gracias señora presidenta señorías buenas tardes el pasado dieciocho de octubre comparecía en la comisión de trabajo y justicia

a la comisión para cuestionarle sobre diferentes aspectos del sistema de justicia que tenemos en la comunidad y entonces

de nueve sistemas procesales en diecisiete comunidades autónomas él nos trasladó pues que era una traba más

del expediente electrónico dentro del sistema de justicia y un problema para trabajar y para comunicarse con otras comunidades autónomas incluso dentro de la propia comunidad autónoma en la actividad diaria incluso con los organismos auxiliares de justicia con la policía con los sistemas de menores

hizo eco además en ese momento de una serie de conclusiones que habían tenido en las jornadas de

en oviedo de este mismo año y en ese mismo sentido esos días se pronunciaron la

conferencia de jueces y juezas decanos de toda españa que se habían reunido en bilbao

de octubre que también exhortaban a que se tenía que crear un sistema

en el año dos mil dieciséis cuál es el problema que en diecisiete comunidades autónomas tenemos nueve sistemas informáticos por decirlo de alguna manera de tratamiento de la información para trabajar y para comunicarse entre los juzgados

y entre diferentes órganos judiciales no solamente de distintas instancias no solamente entre las audiencias provinciales y los juzgados de diferentes órganos menores

audiencia nacional tribunales supremos o las cortes europeas eso tremendamente el trabajo de todos los operadores de la justicia y supone a la larga una carga importante a los ciudadanos porque el principal problema con el que se encuentran es el retraso en las resoluciones de los expedientes judiciales cuando ellos acuden a los tribunales lo que necesitan es una justicia eficaz eficiente y sobre todo

coexistencia de distintos sistemas procesales lo que hace es que la justicia sea mucho más lenta en el mismo sentido se han pronunciado todo los operadores de la justicia lo han hecho

las distintas asociaciones profesionales de fiscales también lo han hecho el consejo general de la abogacía española el órgano superior de los procuradores del país y de la misma manera los representantes de los funcionarios y así en las últimas jornadas que

en el dos mil dieciséis exigía a todos los gobiernos competentes la creación de un sistema procesal único

de todos los operadores de la justicia para conseguir

más rápido es muy importante que sea más barato al tener que coexistir distintos

autónomas que tiene competencias en la materia como la nuestra tiene que invertir ingentes cantidades de dinero no solamente en la creación en el estudio de creación puesta en marcha de estos sistema procesales nuestro justicia

existen en otras comunidades autónomas sino además en el mantenimiento de los mismos mantenimiento que tiene que dar soporte a todos las evoluciones

al menos a nivel de usuario ustedes conocerán son continuas son continuas las actualizaciones de cientos de programas de cientos de soportes que suponen la paralización de estas plataformas con las que nuestros operadores de justicia nuestros jueces y funcionarios tienen que trabajar día a día para evitar que esos problemas estén surgiendo y estén encareciendo

más interesantes y más urgentes hemos presentado una proposición en la que instamos una proposición no de ley en la que instamos

y al gobierno de españa a que colaboren junto con el resto de las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia en la elaboración de un sistema procesal común

interconectar todos los juzgados y todos los organismos auxiliares de todo el país puesto que tenemos

un sistema judicial único que de la misma manera ese sistema nos permita conectarnos con otros operadores de justicia como puede ser las policías no es de extrañar darse un paseo por un juzgado de guardia a primera hora de la mañana y encontrarse con los agentes de la policía autónoma o con los agentes de la policía local que debajo del brazo vienen a traer en papel los atestados porque

de enviarlos telemáticamente y que quién lo recibe pueda reutilizarlos para volver a utilizar esa información para no tener que cargar todos esos datos de nuevo lo que supone horas y horas de trabajo de todos los funcionarios de justicia de esta y de otras comunidades autónomas un sistema único un sistema en el que puedan conectarse todos los organismos todos los trabajadores y todos aquellos que trabajan con la justicia desde fuera abogados procuradores peritos etcétera etcétera esa es la intención de la moción que hemos

que nos va a suponer un ahorro económico importante y la consecución de una justicia más rápida más ágil más cómoda y más eficaz y conseguir uno de los objetivos que se nos han planteado por parte de este gobierno que es la definitiva instauración del expediente electrónico en los juzgados un expediente electrónico en los juzgado un expediente electrónico que la pasada semana o esta misma semana

jefe del tribunal superior de justicia que es una entelequia

con el que tienen puesto que todos tienen que trabajar con expedientes de papel sobre los que se trabaja físicamente y con expedientes electrónicos con los que se trabaja en el ordenador

el que viene del juzgado y el que viene de la fiscalía es decir para la redacción

de iniciativa tienen que trabajar tres veces en papel en el expediente del juzgado y en el expediente de la fiscalía eso supone un atraso no tenemos medios personales suficientes como para que podamos perder el tiempo triplicando el trabajo es una queja de los profesionales

y de procuradores y yo entiendo señorías y para eso solicitó el apoyo de todos los grupos a nuestra iniciativa para que sea un ahorro para
las administraciones públicas muchas gracias eskerrik asko ruíz de arbulo jauna

desde elkarrekin podemos entendemos la necesidad de unificar el sistema de gestión procesal porque facilita la comunicación y

con unos principios básicos de coordinación cooperación y reutilización de soluciones sin embargo

no es la única demanda que hacen los profesionales para poder alcanzar la excelencia en nuestro sistema de justicia recientemente las juezas y jueces decanas de españa

de los principales problemas de la administración de justicia reclaman mejoras y si bien admiten que tenemos un buen sistema judicial muy garantista y de alta calidad aunque poco ágil

que la justicia funciona mal que su organización y funcionamiento no responde a las exigencias de una sociedad avanzada que con los medios que dispone no puede luchar eficazmente contra la corrupción y que todos los gobiernos han tenido siempre más interés por controlarla

para optimizar su funcionamiento los profesionales piden un pacto de estado en materia de justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial que refuerce la independencia a nivel institucional piden entre otros aspectos colaboración entre los distintos poderes del estado un plan de inversiones a largo plazo más allá de una legislatura

un aumento de la planta judicial que nos sitúe en ratios similares a los de los países de nuestro entorno medidas tendentes a evitar

sin que ello suponga mermas del derecho a la tutela judicial efectiva

cuya modificación debe contar con el parecer de la junta de jueces consideran también importante e ineludible la mejora

y creación de servicios comunes especializados en ejecución sugieren también además

por la agencia estatal de la administración tributaria bajo estricto control judicial piden que el proceso se adapte a las directrices que ha desarrollado el tribunal de la unión europea en materia de consumo por eso desde elkarrekin podemos también creemos que hay que compatibilizar todos los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas y en consecuencia proponíamos en nuestra enmienda inicial la realización de un proceso participativo

que pueda ser adoptado por todas las administraciones tanto por las que hasta el momento no hubieran asumido la competencia en la administración de justicia como por las que sí así desde nuestro punto de vista el sistema a implantar debe atender tanto

como a la libertad de aquellas comunidades que ya hayan invertido en sistemas propios que funcionan a otro común o no pero también por un proceso que cuente con agentes y profesionales que forman el sector de la justicia

de la calidad y la eficacia o falta de ellas en los sistemas

y se encamina hacia la implantación de un sistema de gestión procesal único

elaborado por una consultora tecnológica nosotras entendemos que esta medida

que guía su política que en el ámbito de la justicia no es un tema que viene de ahora ya en dos mil once hubo presidentas de varias comunidades autónomas gobernadas por el pp

o se pronunciaron ante el elevado coste de la misma postura que a los ojos de una parte del colectivo que trabaja en el sector

por asumir competencias para presta servicios a la ciudadanía de los cuales

del mismo modo esta decisión ha sido valorada de forma negativa por algunas comunidades autónomas que han sido muy críticas con el citado informe

en las alegaciones que han remitido al ministerio de justicia en la última conferencia sectorial

y quedaron muy claras dos posiciones antagónicas sobre este asunto para nosotras es fundamental unificar criterios coordinarse y cooperar entre todas las comunidades ahora bien el sistema de gestión procesal único solo sería posible si en su momento se hubiera reservado la competencia sobre esta cuestión hubiera sido perfectamente justificable esta reserva pues estos programas informáticos son la cara b de las normas procesales que por definición son de competencia estatal

y cada comunidad autónoma con traspasos en la gestión de medios materiales y personales de la administración de justicia

su propio sistema de gestión procesal el sistema puede tener sus inconvenientes pero entre otras cosas también acerca a la ciudadanía la percepción sobre el modo en que los gobiernos gestionan los servicios y por tanto facilita tanto la percepción

utilizamos los gobernantes el poder que se les atribuye a través de las urnas si el ministerio de justicia

de gestión procesal va a tener que convencer a las diferentes comunidades autónomas

para la creación y desarrollo de su propio sistema de gestión procesal junto con todo el trabajo y esfuerzo empleados en la implantación de los mismos y en la adaptación del personal

para apoyar una iniciativa de programa único con muchas incertidumbres de un futurible que aunque este por hacerse realidad y que exige otra importante inversión de dinero y de tiempo nos parece razonable que haya comunidades que se resistan a cambiar una realidad que funciona

de que algo que se dice es mejor pero que no se puede garantizar existen antecedentes de cooperación desarrollados sobre una misma base a partir de acuerdos de colaboración entre comunidades que cumplen con los criterios de interoperabilidad exigidos y que han sido capaces

sin necesidad de tener un programa por cada cosa todas las utilidades necesarias para el trabajo en los órganos unidades oficinas

hasta la integración del programa de fiscalía pasando por la firma electrónica o la realización de actos de comunicación y presentación de escritos y documentos de forma telemática cosa que el ministerio hasta ahora no ha conseguido ni de lejos con su complejo de programas varios minerva lexnet fortuny etcétera con este escenario

es razonable para nosotras que se permita a las comunidades autónomas elegir sus sistemas de gestión procesal sea el que sea exista ya o se tenga que desarrollar siempre y cuando cumplan con los criterios de interoperabilidad establecidos como también es importante la gestión del cambio la implicación de los usuarios directos de los programas

que el propio programa o programas que se elijan quizá el problema no sea tanto de distribución de competencias que a veces

para ponerme yo sino de que hasta el momento muy pocas veces se ha tenido una verdadera intención de colaborar y cooperar sin embargo desde nuestro grupo parlamentario

partiendo de conceptos como la cooperación o la colaboración no solo desde el ámbito institucional sino también preguntando a los usuarios y a los agentes que día a día

de ahí que nuestra propuesta se basase en unificar sistemas sí pero de llegar a un sistema acordado por lo que valoramos de forma positiva la flexibilidad de los grupos enmendantes que han transaccionado con nosotras para tratar de incluir esta propuesta de nuestro grupo en la enmienda transaccional

que hemos acordado si hay que liderar algo que sea un proceso participativo en el que cada comunidad autónoma pueda poner en común con las demás lo que les ha funcionado y lo que no escuchando a profesionales y usuarios viendo cómo solucionar los problemas de transición de los actuales sistemas a otra común y como bien recogía la propuesta inicial de euskal herria bildu que no sea solo compatible en el estado sino también en el ámbito europeo pero además sería interesante

más allá de la conferencia sectorial de justicia para analizar sobre qué premisa se ha realizado cómo se ha valorado cada uno de los sistemas de gestión procesal

si es de nueva creación o basado en alguno de los que ya están en funcionamiento

así como la opinión de las comunidades autónomas especialmente de aquellas que no comparten el contenido y la conclusión del informe y más allá

creemos al igual que la central sindical independiente y de funcionarios que el informe debería ser público por varias razones que van desde su financiación pública

hasta por razones de coherencia para poder estudiarlo porque si de verdad se quiere llegar a un gran pacto o estrategia nacional de justicia como se llama ahora por la modernización de la justicia

con el proceso y su reforma en definitiva desde elkarrekin podemos apostamos siempre por la colaboración y la cooperación y por eso hoy hemos presentado junto

a los nacionalistas y a eh bildu una enmienda de transacción que espero que salga adelante mila esker eskerrik asko garcía andrea

idiomas informáticos diferentes y eso efectivamente entiendo que es un problema arazo bat da esplikatu izan dute

hay que hacer cambios hay que mejorar pero la cuestión es cómo y partiendo de qué

hacer todo desde otro sistema dejando lo nuestro y yo creo que eso no es

ni conveniente ni necesario porque sería hacer desaparecer lo que ya tenemos con el gasto que ya se ha hecho en esta comunidad autónoma para

para qué señora garcía y comparto con usted toda su intervención casi toda pero hay una cosa que no comparto con usted usted ha afirmado aquí que para que este sistema judicial que tiene españa que es bueno

judicial lo único que comparto es eso que tiene un sistema

me voy a quedar en esa parte de su frase pero sí creo que lo que podemos hacer es mejorar esta cuestión y por eso cuando hemos visto la propuesta

era bueno acordar en esos términos básicamente porque hace dos cosas zeren guretzako oso inportanteak direnak

intenta hacerlas siempre con visión de futuro y desde una perspectiva global y la propuesta que hemos consensuado reúne también aparte de todo lo demás
esas dos condiciones por eso euskal herria bildu va a votar a favor de esa enmienda transaccional besterik ez eskerrik asko

la tarde de hoy debatiendo una propuesta sobre el sistema

con respecto a los beneficios o los errores de los distintos sistemas que coexisten en este momento en el estado

a algo más práctico y más entretenido porque dadas las horas que son compartimos todos y lo han dicho los que han salido y seguramente también lo haga el portavoz del partido socialista cuando salga detrás de mí el que

en las relaciones con los ciudadanos y con las ciudadanas y con los profesionales del derecho lo que llamamos o han llamado ustedes el papel cero mejora la eficiencia de la justicia y por consiguiente

a la ciudadanía a esa tutela judicial efectiva de sus derechos ante los

compartimos que la modernización de la administración de justicia es necesaria

en eficacia conocemos también todos que existen diez sistemas si contamos que el ministerio tiene dos él solito tiene dos verdad y que también compartimos que es necesario avanzar hacia un sistema en común lo que ya no tenemos tanto acuerdo y lo hemos visto también a lo largo del día de hoy es que está convergencia la vemos de una manera distinta porque los socialistas sí que queremos caminar hacía un sistema procesal común

e interconexión de los diferentes aplicativos que ya existen

y con este objetivo ya en el año dos mil once los socialistas aprobamos la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia para definir ya en una norma con rango de ley los requisitos mínimos que de interconexión

y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos pues eran necesarios para garantizar esa tramitación electrónica que tanto defendemos ahora porque sí es verdad

que uno de los objetivos de esta tramitación electrónica

más barata yo me va a permitir que con los

no tenga mucha confianza en que esa sea realmente la intención que se tiene en este

quiero pensar más que es un tema de eficacia y de eficiencia y no tanto pensado en el tema de la economía

porque nos piden que respaldemos este proceso en primer lugar para que los lidere el ministerio de justicia que usted sabe y yo también y no lo vamos a poner aquí sobre la mesa no tiene un historial muy exitoso en esta materia

quiere que respaldemos un aplicativo que no tiene ni planificación ni coste conocido todavía y además nos pide

en el país vasco para mí que es mucho pedir que nos está pidiendo

por qué nos lo piden ahora y la única cosa que conseguía hilar es que el ministerio ha encargado un informe a la quédese con ello

que es como comienza la consultora el informe conocido como informe gafner que debe ser el nombre que ellos tienen que yo pensé estos deben ser de bilbao

del mundo la verdad es que mal comienzo tiene el informe porque usted lo sabe y yo también que tan siquiera se para a analizar los diez aplicativos existentes

siete de ellos y porque incorpora los dos del ministerio el que está en este momento en proceso de fabricación como digo yo en proceso de diseño y el que está implantado no analiza tan siquiera el sistema procesal que tenemos en euskadi

curiosamente los desecha como compatibles queda como compatible curioso curioso aquel al que le encargan quien le paga el informe

no lo tienen compatible resulta curioso y lo que ha provocado este informe es que se presenten alegaciones por todas las comunidades autónomas que han sido analizadas la verdad y sinceramente yo me lo he leído pues no con mucha profundidad

desde mi punto de vista adolecen de un análisis riguroso para lo que en esta materia se necesita usted sabe y todo este parlamento también que

jesús san josé se ha marcado como línea estratégica la consecución de una justicia ágil

para la modernización de la oficina judicial y fiscal y que ha asumido el compromiso de elaborar un plan de impulso de la administración electrónica para la administración de justicia que tendremos el gusto de conocer el breve

que ya está desarrollado e implantado pero que está pendiente de culminar es verdad y lo han dicho también de forma previa y nosotros es la línea de trabajo por la que vamos a transitar no partimos de cero existen diferentes planes de informatización que se han ido

han contado con el respaldo de los sindicatos para apostar por un sistema propio en el cual hemos invertido y todos lo saben muchos recursos económicos y personales no solamente esto es una cuestión de dinero sino también de adaptación al sistema

de confluencia en su aplicación es un sistema integral e integrado que trata de seguir al resto de sistemas que ya se estaban realizando

para evitar errores y mejorar en la eficiencia y en la agilidad y que conecta no solo fiscalía y órganos judiciales sino también otros servicios especializados que aquí se han mencionado

por la borda y es un echar por la borda porque usted ha tirado de la intervención que tuvo el señor ibarra el presidente del tribunal superior de justicia del país vasco pero él nos explicó perfectamente hace pocos días lo que el entendía también lo que no teníamos que echar por la borda y nos decía y le cito textual

que los diez sistemas de gestión no se comunican con la necesaria agilidad y ese es el problema de fondo de tal manera que mientras no se consiga la convergencia de esos sistemas

la convergencia a un espacio común mientras no se consiga eso seguiremos teniendo problemas pero por qué es difícil llegar a ese espacio común

que van a ser útiles en el sistema común y otras partes que no van a serlo

pues vayamos a un sistema único y hacemos tabla rasa se establece un solo sistema único y se implanta a toda la administración de justicia lógicamente es inviable así

intervención por tanto no creo que la transaccional a la que hemos conseguido

y el partido socialista responde un poco a lo que hemos ido

bat hasta su total culminación queremos defender un sistema de gestión procesal común pero basado en la interoperabilidad en la colaboración y la coordinación

de españa como desde el gobierno vasco para que este proyecto llegue a ser una realidad

de su iniciativa parecía pretender un fin a tomar en consideración pero esta primera impresión cambio sustancialmente

y en ello también ayudó bastante leer su parte dispositiva donde al gobierno de españa la exclusividad del diseño del modelo sin tener en cuenta el resto de comunidades autónomas con competencias en la materia esta comunidad autónoma y otras once más

ver que la misma iniciativa literal palabra por palabra y en un corto espacio de tiempo escasas semanas varias concretamente en día que comparecía el presidente del tribunal de justicia en esta cámara por cierto la rioja valencia y canarias sus compañeros del partido popular

ya habían presentado en sus correspondientes cámaras legislativas estas iniciativas como digo se ha presentado por el partido popular en varias de las cámaras legislativas de las comunidades autónomas que tiene asumidas las transferencias de los medios personales y materiales en justicia a título de ejemplo

con los votos del partido socialista de podemos y del partido regionalista de cantabria nos decía que el origen era la comparecencia del señor ibarra pues visto lo visto no lo tenemos tan claror señor ruiz de arbulo antes este panorama he de confesarle que involuntariamente me vinieron a la cabeza las palabras que recientemente pronuncio

es evidente que se trata de una iniciativa que viene de arriba abajo y que está enmarcada en una clara estrategia del gobierno español

el veintidós de septiembre le decía que se trataba de una estrategia nacional de un sistema de gestión procesal

para explicar las líneas generales de su departamento dejó claro que este era un reto de esta legislatura

que no quisieran a pesar de estas declaraciones de hace casi ya un año esta es una iniciativa preocupante como se ha mencionado aquí por la trayectoria recrentralizadora al gobierno popular

a las que antes me refería y de otros portavoces populares además

en el foro adecuado en el seno de la última conferencia sectorial de justicia

la clave para llegar a un acuerdo en esta materia no está en su propuesta de sistema de gestión procesal común y o único sino que está en el segundo párrafo

donde literalmente dice que la apuesta por una justicia del siglo veintiuno ha de ser respetuosa con el diseño institucional del que nos hemos dotado y para ello tenemos que tener en cuenta el articulo ciento cuarenta y nueve uno punto cinco de la constitución los artículos trece y sobre todo el treinta y cinco apartado tercero el estatuto de gernika

donde aparecen de manera explícita los medios informáticos la sentencia del tribunal constitucional número cincuenta y seis barra mil novecientos noventa veintinueve de marzo

avalando las competencias autonómicas en materia de administración de justicia y reconociendo al mismo nivel importante al mismo nivel ambas competencias la estatal y la autonómica en esta materia y finalmente la ley dieciocho barra dos mil once aprobada no por este parlamente sino por las cortes generales

que se sustenta como bien sabe usted sobre las ideas de la compatibilidad y de la

de los sistemas y aplicaciones y que no hace referencia en ningún momento en su articulado a un sistema de gestión procesal común ni mucho menos lo impone sino justamente lo contrario y además crea un órgano colegiado para posibilitar esta necesaria compatibilidad e inter operablidad el comité técnico estatal de la administración judicial y electrónica donde euskadi está presente y forma parte

entre los distintos programas informáticos por todo ello y sin entrar en otras valoraciones

un ahorro que va a suponer un ahorro importante para esta comunidad si nos lo puede cuantificar cuál ha sido la experiencia de los sistemas utilizados por el ministerio de justicia ya digo

para nada era respetuoso con el diseño institucional y legal vigente y por eso con el grupo socialista

fundamentada básicamente en la puesta en valor de nuestro propio sistema de gestión procesal y en destacar los compromisos adquiridos por el gobierno vasco en la materia

los sucesivos gobiernos han realizado un gran esfuerzo desde el punto de vista técnico y económico

los profesionales también han realizado un esfuerzo y realizan un esfuerzo importante no solo para implantar el sistema sino también para trabajar día a día con el sistema justizia bat

y en esta misma semana hemos podido comprobar en la comparecencia también en la comisión de trabajo y justicia de la señora fiscal superior de la comunidad autónoma como además de explicitar algunos problemas que no se pueden negar

la reciente implantación del sistema de gestión procesal vasco en la jurisdicción de menores no estamos dispuestos a renunciar a la competencia de poder dotarnos de un sistema de gestión procesal propio acorde con nuestras necesidades y tampoco estamos dispuestos como no lo estarán otras comunidades autónomas a tirar a la basura todo este trabajo desarrollado concretamente en euskadi

somos conscientes de la necesidad de que estos sistemas sean compatibles pero esto como digo no implica que haya que echar por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora orain

el gobierno vasco como decía la señora castelo el departamento de trabajo y justicia se ha comprometido para esta legislatura con un sistema judicial moderno

potenciando el modelo de justicia de proximidad y coordinación judicial por ello y para ello el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista y el partido socialista recoge en esta materia entre otras cuestiones el compromiso de completar el proceso de implantación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y la implantación de la interoperabilidad

y el resto de sistemas de gestión procesal que operan en el estado y en europa para reforzar esta labor el departamento ha creado la dirección para la modernización de la oficina judicial y fiscal

justizia bat es un referente del sistema informático de gestión procesal reconocido a nivel estatal euskadi además de ser pionero siempre ha ido liderando las herramientas informáticas y la estandarización de las mismas de cara a esa necesaria

lan ildo horri ekin nahi diogu y en esta defensa de nuestro sistema propio y específico

para que también podamos defender un sistema de gestión procesal común pero no único que respete nuestro sistema para todo el estado y como decía incluso a nivel europeo

elkarrekin podemos y euskal herria bildu a los que agradecemos el apoyo a la misma besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

voy a empezar por la última intervención señor zorrilla me alegro mucho de que lea una primera una segunda incluso una tercera vez

que se lea una primera una segunda y una tercera vez mi intervención para que encuentre el verdadero sentido el sentido literal

yo no he hablado de un sistema único que hagan otros yo he hablado de un sistema común

es justizia bat que lo adopten todas las comunidades autónomas

y efectivamente haciendo una reflexión sobre las palabras del señor ibarra

una comisión de expertos que deje el lado la visión política en este asunto y que se dediquen a buscar las cuestiones que funcionan bien y las que funcionan mejor

y de entre todas ellas busquen la creación de un sistema y la financiación para un sistema que sea común y que sea global señora garcía efectivamente estamos pensando

y en colaboración pero es que la cooperación y la colaboración no solamente son de su grupo es que es una obligación para todas las administraciones públicas como la eficacia como la eficiencia

en este caso no se está incumpliendo porque lo que no se está incumpliendo es la ley a la que usted ha hecho referencia señora castelo la disposición adicional tercera de la ley once barra dos mil dieciocho decía que efectivamente había un plazo de cuatro años para trabajar en la

y no se ha hecho nada nadie ha puesto voluntad por qué porque los sistemas

la enmienda que nos han presentado el acuerdo de muy buena voluntad que nos han traído todos los grupos esta tarde es un oxímoron no podemos trabajar en un sistema común

terminar de implantarlo por qué porque a futuro en ese mundo global que decía la señora garcía ese sistema no funciona porque los demás no pueden conectarse

usted lee mucho las intervenciones y las iniciativas pero yo le recomiendo que hable con abogados y procuradores tenemos el mejor sistema el más prestigioso por cierto señora castelo

de la mano de la señora mendia hablaba de este sistema decía auténticamente bárbaras y usted debería revisarse la hemeroteca y ver qué es lo que ocurría con ese sistema que ahora defiende con tanto ardor

cariño señor zorrilla si usted hablara con abogados y procuradores sabría que el sistema operativo que tenemos perdón que el sistema procesal que tenemos en esta comunidad solamente es apto para un sistema operativo

windows no sirve para los sistemas operativos libres no sirve para apple

yo no sé qué opinará la autoridad vasca de la competencia de eso pero esta cercenando el mercado para los sistemas operativos y solamente se puede acceder desde el buscador de internet más antiguo y más obsoleto y por lo tanto el menos seguro que es

y ese es el mejor sistema y el que vamos a exportar al mundo mundial y que es un referente

que lo queremos nosotros es un sistema que sea referencia europea de acuerdo pues creemos un sistema para un sistema operativo común no único que tome lo mejor de todos los que están funcionando en las diferentes comunidades autónomas y de esa manera efectivamente conseguiremos abaratar los costes en cuánto

en la barbaridad de dinero que se ha gastado esta y otras comunidades autónomas en crear un sistema propio que no acaba de funcionar bien que no sirve

de los funcionarios ese es el ahorro que vamos a poder conseguir a futuro estamos hablando de un proyecto no a un año dos años sino a cinco a diez años

intercomunicado para el que los sistemas que tenemos ahora

crear uno nuevo muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

zuk esan duzuna y lo que nos ha dicho es que usted lo que plantea es un sistema común entonces la pregunta que yo le hago es si eso es así y eso que usted plantea no es incompatible con el propio todos los demás grupos

por qué cuando hemos introducido la palabra propio usted ha dicho que no firmaba esa es la respuesta que usted no ha contestado y entonces la conclusión es que usted no quería eso besterik ez

bueno yo no sé porque me ha querido usted euskaldunizar el nombre o no sé o asturianizar no tengo muy claro soy castelo que decir es sencillo ni castelu no castelo o sea gastelu en todo caso si usted quiere

pero bueno usted me dice sistema común

que ese sistema es uno para todos pues eso es único o sea común uno para todos que es lo que usted dice uno para repartir entre todos eso es un sistema único y yo la verdad no sé si quiere usted que yo me crea o quiere usted hacer creer a todo el mundo que en este momento y con el avance de tecnologías que van superándose

imposible técnicamente hacer compatibles sistemas se ha compatibilizado absolutamente de todo

de este tema en otros sitios pero yo no quiero en este momento estar comprando argumentos de los lobbies

de las empresas de auditoría informática de las empresas de mantenimiento informático y de programación informática no quiero y estoy convencida que se puede superar los

déficits técnicos de la interoperabilidad y la mejora de cualquier sistema informático vigente

nos dijeron y nos hablaron con cierto ardor de la agencia estatal pero lo que tiene la ley del dos mil once es un comité técnico

nombra miembros el ministerio de justicia y las comunidades autónomas sino también el consejo general del poder judicial y la fiscalía por tanto

jurídicos y yo la verdad no he alagado vamos cualquiera diría aquí que estoy ensalzando el justizia

usted y yo conocemos y también otros parlamentarios cómo ha funcionado y cómo ha ido mejorando el funcionamiento de justiziasip y si no lo dijéramos pues no seríamos justos qué le queda mucho por hacer sí

sí pero que vamos dando pasos pues también pues también y yo no sé a usted pero a mí sí se me ponen los pelos de punta de pensar en migrar a un sistema totalmente distinto

cuando les da por cambiárnoslo el proceso de implantación y adaptación al mismo es un coste muy importante que muchas veces no se

es que todos vayamos al mismo sitio y no que el mismo sitio nos coja a todos fundamentalmente

pues lo que hemos hecho ha sido transaccional con el resto de grupos en los que hemos conseguido saber que era común y único o común y propio y por tanto

no respaldaremos la propuesta presentada eskerrik asko castelo anderea

eskerrik asko me quedo con dos cosas que me ha dicho el señor ruiz de arbullo sobre el sentido literal bueno pues sí le he escuchado además le he escuchado además de leerle varias veces le he escuchado con mucha atención y también me decía que no se quede

es el parlamento vasco creo que es una cámara política y otro tipo de interpretaciones pues pueden complementar pero yo creo que exceden de ello por eso le decía

la estrategia que había detrás de todo esto que y voy a ir literal al diario de sesiones del parlamento de cantabria donde su portavoz

al que el actual marco competencial ha llevado a la administración de justicia en materia de tecnologías

superando las circunstancias particulares de cada administración y priorizando lo común frente a lo particular le he dicho también antes literal lo que decía el señor ledesma en las cortes de aragón estrategia nacional de un sentido de gestión procesal único su portavoz de la rioja decía que visto que los esfuerzos para mejorar la interoperabilidad de los nueve sistemas actuales

proponemos un cambio en la estrategia para establecer un sistema de gestión común

no le voy a recordar las palabras que dijo en una conferencia el señor catalá el señor ministro catalá pero sí le voy leer una respuesta oficial del gobierno

que dice que el gobierno a través del ministerio de justicia está estudiando la posibilidad de avanzar hacia un sistema de gestión procesal común que sea capaz de superar el concepto de interoperabilidad para lograr alcanzar el de la integración por lo tanto yo creo que el sentido literal está muy bien pero el objetivo final también hay que verlo después detrás de la literalidad hombre

en cuanto a sistemas en cuanto al funcionamiento del sistema justizia bat

pero antes hemos hablado de la reunión de la conferencia sectorial el veintiséis de julio pues al día siguiente como bien sabe usted el veintisiete de julio hubo un fallo de seguridad de sistema lexnet del ministerio de justicia

que dejó prácticamente al descubierto toda la documentación de cualquier expediente judicial

y voy a terminar con una valoración de esta estrategia nacional que no la hacemos nosotros sino que he encontrado de la asociación judicial francisco de vitoria que dice para la asociación judicial francisco de vitoria el ministerio está anunciando un objetivo que sabe o debe saber que es imposible de realizar a corto

que para lograr este objetivo debe necesariamente contar con las comunidades autónomas que tienen transferida competencias en materia de justicia es decir que el ministerio habla de un proyecto que implica competencias que no son suyas sino que además estas las comunidades autónomas como decíamos antes nosotros

en sus propios sistemas informáticos el sistema informático único nacional es una quimera por eso nosotros planteábamos desarrollar el nuestro nuestro propio sistema de gestión procesal

y a trabajar en la compatibilidad e interoperabilidad con el resto de los sistemas del estado y de europa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna